kokatuko dira tercer lugar quería también hacer una reflexión sobre el acuerdo entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco acuerdo por el que el gobierno se congratula el gobierno

han realizado en él se contienen una serie de elementos creemos nosotros desde el gobierno muy importantes para la reactivación económica del país

en las diferentes áreas específicas como pueden ser infraestructuras en tecnología en innovación pero tiene un período de vigencia que es año dos mil catorce año dos mil dieciséis

y a los efectos que la reforma fiscal con las características que tiene el sistema tributario nuestro de liquidación

el gobierno se congratula que ambos partidos hayan logrado ese acuerdo en el área económica pero en lo que más concierne al día de hoy en el

a cumplir aquellas partes o áreas del acuerdo

expresamente o específicamente al gobierno porque hay otras áreas que conciernen a ambos partidos políticos o incluso a otras instituciones como pueden ser juntas generales o diputaciones forales en lo que concierne al gobierno nosotros qué hemos visto en este acuerdo

con lo que este consejero expuso en el debate de fiscalidad del pasado mes de febrero objetivos de la política fiscal principios por los que ha de inspirarse y características del mismo

el acuerdo con el partido socialista que ha hecho el partido nacionalista vasco pretende obtener

otorgar en la medida de lo posible suficiencia financiera a las instituciones ayuntamientos a diputaciones

pues para poder garantizar adecuadamente el modelo vasco de protección social

el sistema educativo el sistema sanitario y el sistema de la protección social contra los más necesitados ese es uno de los objetivos que yo creo que este acuerdo entre

y en segundo lugar está el de impulsar la actividad económica y la creación de empleo

ambas políticas y eso enlaza también con lo que este gobierno ya ha diseñado como instrumento de política económica

en los próximos años a corto y medio plazo documento de análisis de políticas públicas que todos ustedes conocen porque es público y se les ha remitido al parlamento

pero también incentivar la economía con la creación de empleo en ese acuerdo se contenía y contiene alguno de los principios que yo manifesté en el debate del mes de febrero el buscar una reforma fiscal que se caracterizara en los siguientes principios más justa

más progresiva y que diera suficiencia por lo tanto el gobierno comparte

como saben sus señorías yo tuve oportunidad de exponer en la intervención que tuvimos el pasado mes de febrero en esta cámara

de la reforma fiscal que yo también anunciaba el pasado mes de febrero que eran

por un respeto escrupuloso a los ámbitos competenciales de las diferentes instituciones instituciones comunes instituciones de los territorios históricos

una reforma fiscal que diera suficiencia financiera y en tercer lugar una reforma fiscal en acuerdo interinstitucional en el que subyace un acuerdo político bien objetivos principios y características de la reforma fiscal compartimos esos elementos del acuerdo entre ambos partidos

en esta cámara en cuarto lugar como gobierno quiero hacer referencia a la importancia que nosotros damos y le reitero como he dicho anteriormente al compromiso del lehendakari para cumplir aquellas partes que nos conciernen en la materia

porque el compromiso del gobierno es el de participar activamente en un órgano interinstitucional que creó esta cámara ese órgano interinstitucional se llama el órgano de coordinación tributaria creado por esta cámara pero que no es un órgano del gobierno es un órgano en el que el gobierno participa con otras instituciones como son

que asumimos desde el gobierno de que se desarrolle desde el punto de vista de la interinstitucionalidad una labor

al consenso la coordinación y la colaboración entre las instituciones para establecer un sistema tributario que tenga

ese es un trabajo importante que el legislador otorgó en su momento a ese órgano interinstitucional y nosotros dentro del compromiso del gobierno que tenemos

lo vamos a cumplir también hay otro compromiso importante

donde en el seno de ese órgano interinstitucional se acuerda

la fijación de una comisión dependiente del mismo que fije las líneas de un plan conjunto de lucha contrael fraude a nivel de comunidad autónoma una comisión específica en el seno del órgano de coordinación tributaria y que nosotros como gobierno nos comprometemos también a impulsar en el ámbito de lo que supone la ley

de organización del órgano interinstitucional en cuestión quería también señorías hacer

siguiendo en esta línea en un quinto espacio de reflexión

sobre la coyuntura en que nos encontramos en este momento en nuestro marco tributario

reforma fiscal moderada el ámbito tributario que nos circunda

estatal tiene unas características que todavía

que grava los beneficios de las sociedades mercantiles todavía tiene unos niveles de intensidades de presión fiscal superior es cierto que con esta reforma se

y de las sociedades pero todavía por debajo de lo que existe

para las empresas en territorio común tanto en amortizaciones o en libertad de amortización en compensación de bases imponibles negativas

que nosotros hemos modulado de una manera que compatibilicemos la obtención de recursos pero con estimulación de la economía y que son mucho más gravosas en territorio común que en territorio vasco en los tres territorios que conforman la comunidad autónoma tanto en lo que han normado las juntas generales de gipuzkoa como las de álava como las de bizkaia

con todas estas características de elementos que he dicho a la hora de la conformación de lo que es la estructura del impuesto de sociedades pero también en la renta de las personas físicas puesto que en el estado desde este mismo año no hay posibilidad de que ningún ciudadano que adquiera una vivienda habitual este año tenga una deducción eso ha desaparecido en territorio común

el gobierno valora positivamente las líneas que se contienen de compromisos en el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

garantizar recursos para el modelo vasco de protección social con

en un año todavía duro muy duro este año el año que viene también va a ser duro

en el debate de política general y así es la realidad pero estamos trabajando hemos trabajado con ustedes porque ambos grupos han pactado

de reactivación económica pero también el gobierno está abierto a otras sugerencias de

oportunidades tendremos de tratar estas cuestiones con próximos debates en materia presupuestaria que va a haber en la cámara

en relación a la coyuntura en la que nos encontramos en nuestro sistema tributario vasco

insertar en el concierto económico itun ekonomikoaren edukinean sartzea

tanto la parte financiera de lo que es el concierto económico como la parte tributaria del concierto económico evidentemente está ligada con el sistema tributario

el planteamiento y la línea financiera que marcan los presupuestos generales del estado porque tiene una ligación nuestra relación financiera de euskadi con el estado con las características de los presupuestos del estado ahí tenemos en este momento estamos trabajando la adaptación del concierto económico en

y que darán mayor recaudación y mayor suficiencia sistema institucional desde ayuntamientos hasta el gobierno vasco como son tributos relativos en materia de juego en materia de producción de la energía eléctrica en materia del gravamen complementario especial de loterías y apuestas

la concreción de la reconcertación relativa al impuesto especial de hidrocarburos en cuanto a la venta minoristas de hidrocarburos también el impuesto en este momento

una regulación en cuanto a su recaudación pero que está vivo de depósito de ciudadanos en las entidades financieras en las entidades bancarias así como el impuesto sobre la emisión de gases fluorados contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera ese es un elemento

para adaptar actualizar y tener bien armado nuestro sistema tributario vasco y

sobre el régimen tributario de euskadi creo que merece hacer una reflexión de contexto también de cómo se ve fuera y qué

hace pocos años todavía se estaba poniendo en tela de juicio que si

un régimen tributario de carácter general o tenía que ser una adaptación o una dependencia con el sistema tributario del territorio común eso como saben muy bien sus señorías se zanjó

de la unión europea que tratando una cuestión de prejudicialidad planteada por unas instancias judiciales españolas entendió que el sistema tributario que tenemos las instituciones vascas cumplía con los parámetros que la misma unión europea en

y era el que exista una entidad política como es euskadi con un reconocimiento de autonomía institucional como lo tiene en la constitución

las instituciones vascas tuvieran competencia para poder regular un sistema tributario y en tercer lugar que derivada de esa regulación de un sistema tributario

compensatorios por parte de las instituciones centrales del estado a la comunidad autónoma de euskadi derivada de una regulación pues que pudiera ir en un determinado sentido distinto al que tiene el estado cumplidos esos requisitos yo creo que es importante resaltar

de la ley del concierto económico en ese sentido

con esta reflexión creo que después de treinta y tres años de autogobierno el sistema institucional vasco en materia tributaria se ha caracterizado por dar suficiencia por dar estabilidad por dar bienestar social por cierto todos los partidos políticos

en las haciendas forales en diferentes periodos de la historia

y han sabido los responsables políticos de diferentes partidos acordar consensuar pactar

de hecho los indicadores el estándar de calidad de nuestro sistema económico

es en este momento de gran calidad en cuanto a protección social

en cuanto a estándares y ratios de investigación desarrollo e innovación en cuanto en definitiva

un reconocimiento a la labor de las instituciones forales vascas de este parlamento y del gobierno vasco que a lo largo de estos años han realizado un trabajo importante

partidos políticos por lo tanto el sistema tiene viabilidad pero

con la conjugación de los elementos que he dicho anteriormente objetivo suficiencia

justicia y equidad y sobre todo sustentado en el acuerdo interinstitucional

contestar o aclarar siquiera brevemente a todos los que han intervenido

si no estaríamos perdidos en fin le reconozco su contumacia en este aspecto es verdad

que era cómo se va aplicar esta reforma y con qué método a partir de que

generales pues en primer lugar con inteligencia política y con espíritu de consenso porque esto tendrá que ir a cada una de las juntas generales de cada territorio y veremos a ver lo que aquí ha sido una especia de ejercicio de autoafirmación de cada cual en sus propias

como de bildu se convierte después cuando llegue el momento de la votación concreta y de la negociación que se pueda establecer primero esta tarde y luego allí en un ejercicio de inteligencia y de sentido común y de responsabilidad con el país pero le diré también que en este acuerdo

de esa famosa ley de armonización y coordinación fiscal nunca aplicada en este parlamento hasta este momento por cierto también recoge la posibilidad de que si se produce desarmonización en algún territorio y esto es apreciado así por el órgano de coordinación tributaria

y aprobada y que será es así de obligado cumplimiento en las tres juntas generales de cada territorio

no se nos vuelva de repente foralista y le parezca que este tipo de no se deben producir en este parlamento pero pasando ahora al señor damborenea al que no le he entendido nada cuando ha empezado su intervención

tronando como júpiter tonante porque este acuerdo que íbamos a tomar hoy en este parlamento

iba arruinar la ley de territorios históricos era un ataque directo a la foralidad y usted sale a decir aquí que esto no vale para nada que esto es un paripé que esto es un pago político que le hacemos al pnv no en qué quedamos o lo uno o lo otro

no pueden ser no pueden ser no puede ser que aquí nos estemos cargando el país y usted diga esto no vale para nada es para entretenerse

y después le voy a hacer una recomendación de algo que ha dicho usted que me parece absolutamente tremendo y peligroso esto es un acuerdo en beneficio de los políticos

acuerdo en beneficio de los políticos pero qué clase de discurso populista y antidemocrático es ese que a uno le recuerda mucho aquella frase que dijo uno desde el poder

sabe de quién le hablo verdad señor damborenea pues a eso suena

pero que se hace con la voluntad de que sea beneficioso para la ciudadanía vasca

de tipo demagógico tan del gusto de la derecha en este país y luego entramos en el discurso de siempre de la derecha no me ha sorprendido nada la bajada de impuestos la subida de impuestos a ustedes les dan un miedo tremendo los impuestos

falso absolutamente falso y además escapista porque a la vez que dice usted eso a la misma vez aprueban repagos farmacéuticos y sanitarios que eso sí que son injustos y que son indiscriminados y a la vez a la vez que hacen eso suben las tasas académicas bajan las becas para los estudiantes y a la vez que hacen eso incluso intentan que paguen la quimioterapia los enfermos que tienen cáncer eso sí es ir contra las clases medias

con pocos recursos porque lo que usted no dice en ningún caso es que si usted plantea una bajada de impuestos

ni para beneficio de los políticos como usted dice son para devolverlos a la sociedad claro que aquí tenemos usted y yo probablemente una muy diferente concepción

usted interpreta la política fiscal de una manera que nosotros no

pero sobre todo la fiscalidad es un elemento de redistribución de la riqueza para que las sociedades sean más decentes y para que quien no tiene posibilidad de cubrirlos por sí mismo se le atienda desde los poderes públicos y como he dicho antes para que cada cual pague según lo que tiene

es otra cosa muy distinta y si quiere hacemos comparaciones con cualquier país europeo quiénes son las sociedades más avanzadas

los países nórdicos con la presión fiscal bastante más alta que la vasca y que la española son las sociedades más avanzadas y además las que más invierten

ese es el modelo social que yo defiendo pero el modelo social se mantiene

y no de otra manera luego usted lanza acusaciones falsas como la de las entidades de previsión social y las aportaciones

pero quién va a tener que pagar más señor damborenea aquellos ciudadanos vascos que aporten doce mil euros al año cuando van mediante convenio y quién se puede permitir el lujo en este país con una nómina de destinar mil euros al mes a un plan privado de pensiones señor damborenea póngamelos usted en una lista que le cabrán pocos

un ciudadano normal de este país puede destinar con la que está cayendo quinientos euros todos los meses de las necesidades vitales para pagarse un plan privado de pensiones eso es una falacia eso afecta a los que afecta que no son muchos

a la sociedad porque al resto a los que no llegan a ese tope no se les toca

y usted lo sabe perfectamente y luego se escandaliza usted con el impuesto de sociedades no entiendo por qué

dígamelo le parece mal creo que no verdad de la misma forma que un trabajador paga sus impuestos un empresario pagará los que le corresponde en función de su beneficio no

se le dice que tiene que aportar una pequeña parte por cierto le recordaré

se propone en esta reforma fiscal aquí en euskadi es verdad que se les quitan deducciones y se simplifican desgravaciones por ejemplo no se permite

de un coche de lujo o que se pasen facturas en comidas de restaurante de alto standing eso se elimina le parece a usted mal que se eliminen esas deducciones

las que tengan beneficios paguen al menos un trece por ciento

que pueda permitir que se aporte a las solidaridad común y además que siga funcionando la empresa creo que no luego estamos con

que en fin parece que ahora pone pegas al asunto de la armonización fiscal incluso critica cómo se ha llevado aquí el procedimiento mediante un acuerdo entre dos partidos que firman un texto

exactamente igual hicimos un acuerdo político con ustedes y después trasladamos ese acuerdo a las juntas generales de gipuzkoa

que es el acuerdo que a nosotros nos hubiera gustado no qué se podía haber ido más allá probablemente pero como estamos hablando de una armonización de impuestos en todo el territorio vasco pues se trata de encontrar el lugar de encuentro suficiente para que mejorando sustancialmente porque se mejora sustancialmente la situación fiscal de alaveses

podamos acordar ese modelo después ustedes ponen observaciones de otro tipo como el del estatus jurídico el de la soberanía que por cierto no se planteó en la negociación con el partido socialista en gipuzkoa en ningún momento

en la negociación y hablan también del cambio del modelo económico

señora beitialarrangoitia hay que cambiar el modelo económico y mientras tanto

esperamos a que ustedes ganen las elecciones en alemania o dirijan el fondo monetario internacional para que nos expliquen qué es de verdad la revolución social en este país o empezamos a usar

y empezamos a cambiar las cosas y a ir avanzando en un camino que no hemos llegado al fondo

sustancialmente la situación que teníamos hasta el momento en los territorios de álava

en las respectivas juntas generales se lleve esta propuesta que parece evidente que es

esta propuesta y si no me tendrán que explicar por qué permiten que se apruebe otra situación distinta bastante más regresiva que la que planteamos en esta reforma

partidistas y de fijación de criterios políticos de cara a su parroquia
hagamos el esfuerzo de pensar en los ciudadanos vascos eskerrik asko pastor jauna

tenemos algo que decir esan duzu eta bai maneiro jauna

hain justu be hauxe esaten zen el parlamento insta a las administraciones competentes de la comunidad autónoma vasca a la creación de una comisión

en la elaboración y seguimiento de directrices que se realizan anualmente en materia de lucha contra el fraude fiscal eta zuk honen kontra

no se ha hecho nada para reducir el gasto

reduce su estructura institucional vamos a pasar de cuarenta y dos sociedades públicas a veintiocho de ciento veintitrés sociedades participadas a ochenta y seis de una estructura directiva de doscientos treinta y seis personas a ciento ochenta y nueve nik uste dut ezer

damborenea traer un pacto que lleva un año en gipuzkoa es lo que usted nos ha dicho no señor damborenea esta es una propuesta de eaj pnv y del partido socialista que traemos aquí

es una propuesta para euskadi para los tres territorios históricos por cierto a bildu no le gusta nada por blanda por suave por tanto

su opinión subir los impuestos linealmente a todo el mundo el partido popular quitó linealmente a todo el mundo la deducción

pobres de clase media a todos linealmente subir los impuestos no es nuestra propuesta

ahora tenemos que bajar los impuestos tienen mucho margen

y aun así y todo tienen muchísimo margen porque el partido popular la reforma fiscal y en la fiscalidad que tienen territorio común usted sabe y le voy a decir en algunos casos cuál es el margen por ejemplo que podría tener solo un par de datos por ejemplo en la escala de ahorro se propone

cuando ustedes tienen un veintisiete por ciento

en la deducción de vivienda que usted critica y se lo hemos oído en varias ocasiones en los medios de comunicación

desaparece por completo para todo el mundo jóvenes familias numerosas clase media para todo el mundo directamente fuera

en la escala de la base general ustedes tienen una tributación en la propuesta y en gipuzkoa se plantea un cuarenta y nueve por ciento y ustedes tienen un cincuenta y uno por ciento para rentas superiores a ciento setenta y cinco mil euros

a partir de trescientos mil ustedes tienen mucho margen por eso yo confío realmente en que contaremos finalmente

en territorio común en el tipo en el ahorro usted dice que se ha subido le he dado el dato se lo vuelvo a recordar

y en territorio común veintisiete por ciento a partir de veinticuatro mil y veinticinco por ciento para rendimiento de seis mil a veinticuatro mil euros me preguntaba

cuál era la razón por la que el impuesto de patrimonio no estaba incluido en el acuerdo firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista como usted bien sabe

el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que recientemente se ha aprobado y por tanto no había razón de

en caso de que hubiera alguna desarmonización será

quien tendrá que pronunciarse en ese sentido detectar los elementos sustanciales donde hay desarmonización

propuestas para la posterior armonización dice que nos movemos hacia allí dice que nos estamos moviendo hacia allí hacia la izquierda en materia fiscal pero sabe lo que pasa es que todos ustedes están hacia allí porque vamos y están estos y ustedes están mucho más a la izquierda que bildu en materia fiscal ustedes están mucho mas a la izquierda en materia fiscal que bildu

a lo lejos de la izquierda el pnv hacia delante el pnv va hacia delante y queremos que en este camino

recorramos todos juntos modernos sí señor damborenea hemos

que nos movemos como siempre lo ha hecho el pnv para negociar y poder llegar a acuerdos en este y en otros ámbitos y les pedimos al resto

voluntad de acuerdo y eso exige dejar pelos en la gatera no tenga miedo de perder el pelo porque vuelve a salir no hay ningún problema

a algunos no les vuelve a salir pero en el sentido metafórico sí es el camino que el pnv siempre

hablaba usted del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados siete por ciento es lo que se propone siete por ciento es lo que tienen en territorio común

que nosotros tenemos que tener armonización entre territorios y también armonización con los territorios circundantes

por la reforma esta que los que están nerviosos son los funcionarios mire soy funcionaria en excedencia le puedo asegurar que pocos funcionarios ganan más de noventa y uno mil más de cien mil

y poca gente trabajadora gana más de eso

pero que el común de los mortales de esta comunidad no tiene más de treinta mil euros de de ahorros

creo que debo decir algo y contestar al señor damborenea en relación a algunas de las cosas que usted ha planteado porque efectivamente es muy duro

y para un ciudadano vasco que venga alguien aquí a decirnos que las medidas de política económica impulsadas por el gobierno de españa

y que a la vez critique algunas de las cuestiones que aquí se plantean en esta reforma fiscal nosotros no vamos a defender esta reforma fiscal porque efectivamente no es la nuestra aunque veamos algunas medidas positivas no lo negamos

pero en fin que usted critique determinadas medidas fiscales cuando ya sabemos lo que ha hecho el gobierno de españa en el conjunto de españa pues es ciertamente

ustedes arrasan a impuestos al conjunto de los ciudadanos suben impuestos al conjunto de los ciudadanos

y se quejan de que aquí pueda haber una subida determinados ciudadanos que son efectivamente los que más ganan es ciertamente sorprendente que ustedes no se han dedicado a otra cosa en los últimos años que impulsar subidas de impuestos algo a lo que efectivamente negaron en un principio algo que supuestamente pero esa es la realidad y critican que aquí se pueda introducir algún incremento en determinados tramos que únicamente afectarían a determinados impuestos es decir

para todos los ciudadanos y resulta que aquí ustedes vienen a criticar la deducción por vivienda se limite o haya o contenga determinadas limitaciones es decir ustedes implementan subidas de impuestos recortes sociales

y ponen ese ejemplo como el modo en que tenemos que salir de la crisis económica me parece ciertamente lamentable nosotros no queremos ese modelo

en el congreso de los diputados no se puede implementar subidas de impuestos desde el gobierno de españa y venir aquí al parlamento vasco a decir que hay que bajarlos no parece demasiado coherente y por otro lado

en usted durante estos cuatro años según usted las medidas que nosotros proponemos para luchar más y mejor contra el fraude fiscal están todas ellas aprobadas

propuestas claramente novedosas sin ir más lejos la medida de poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y otras que nosotros hemos propuesto durante estos años y que estarán ahí en esas propuestas de resolución

se apliquen ya en álava y en todo caso la realidad es que ustedes cada vez que hemos venido planteando

ustedes votaban en contra esa es la realidad nosotros

obviamente llevamos pidiéndola cuatro años esta no es en absoluto nuestra reforma fiscal pero insisto en que tiene algunas medidas positivas y en función de las proposiciones de resolución que planteen los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos podríamos apoyarlas no tenemos ningún problema en por ejemplo apoyar la supresión de determinadas deducciones en el impuesto de sociedades la puesta en marcha

por cierto esa propuesta de creación de comisión para la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que la recuerdo perfectamente y que se debatió aquí el mes de marzo fue también votada en contra por parte del grupo socialista porque queríamos ir más allá y en todo caso

señora gorospe en los últimos meses o lo que viene decidiendo o haciendo o proponiendo supuestamente en los últimos meses mire hacia atrás

una reforma fiscal en profundidad y a impulsar medidas de lucha contra el fraude esa es la realidad no mire únicamente lo que ha pasado aquí en los últimos cinco o seis meses mire también lo que hemos dejado de recaudar y el fraude que hemos permitido por no haber impulsado determinadas medidas ya digo esta reforma fiscal

y tiene en fin varios problemas por un lado no hay suficiente progresividad en determinadas medidas que se plantean y por otro lado algo que a nosotros nos parece ciertamente importante es que no se avanza

reducción del gasto innecesario señora gorospe en euskadi a día de hoy sigue habiendo gasto superfluo gasto innecesario por una parte

que habría que modificar y por otro lado el sector público societario ustedes en los últimos meses han planteado promesas pero básicamente no han hecho nada

la reformulación del gobierno para reducir altos cargos no a parte de eso hay muchísimas cosas para hacer la reducción drástica de ese sector público societario se han movido ustedes se mueven a veces para salvaguardar sus intereses pero todo esto que se tenía que haber hecho antes y que sigue pendiente se podía haber hecho mucho antes reforma del entramado institucional reducción drástica del sector público societario esos centenares de entes que siguen pululando

ingentes cantidades de dinero y lo cierto es que en ese pacto global que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi han firmado pues renuncian a llevar a cabo todas esas medidas que nosotros consideramos absolutamente indispensable

a que las competencias fiscales pasen de las juntas generales de los territorios históricos al parlamento asunto señor consejero que no está en absoluto zanjado y que se seguirá debatiendo en este parlamento y en otros parlamentos cada vez con mayor porque es evidente que el entramado institucional vasco no tiene ningún sentido antes o después si el modelo foral no se cambia señor pastor antes o después

pues habrá descoordinación fiscal y tendremos políticas fiscales diferentes para los ciudadanos vascos en función del territorio histórico que

por lo tanto ese es el modelo foral que nosotros pensamos que hay que

que blindar y mantener hemos venido reclamando una reforma fiscal y seguimos defendiendo una reforma fiscal que tenga como objetivo hacer que la fiscalidad sea más justa y más progresiva

más debe pagar que suponga una distribución más justa de las cargas y que sirva para sustentar el estado del bienestar las políticas sociales el impulso

impulsar recortes sociales esto es lo que hemos venido defendiendo durante los últimos cuatro años señora gorospe ustedes ahí tienen muchísima responsabilidad

y han pospuesto este asunto hasta que sus intereses partidarios han planteado otra cuestión

y seguimos diciendo que somos partidarios de que puedan incrementarse determinados impuestos sí lo llevamos diciendo cuatro años pero para garantizar el estado del bienestar la sanidad la educación

no para sostener el elefantiásico modelo foral actual ni para sostener un gasto institucional a todas luces excesivo es decir

una reforma fiscal que sirviera para obtener más recursos públicos como una reducción del gasto incluyendo la racionalización del entramado institucional y la reducción del sector público societario esto no se plantea en esa reforma fiscal

absoluto y nosotros pensamos que la reforma fiscal tiene que ir acompañada por un compromiso del gobierno para gastar menos y gastar mejor reducir eliminar todas esas cantidades de gasto superfluo absolutamente innecesario

nuestras propuestas de resolución recogerán básicamente todas estas propuestas lógicamente no sé si tendremos tiempo estamos dispuestos al acuerdo con el resto de partidos

las competencias fiscales a día de hoy residen en las juntas generales de los territorios históricos en todo caso este debate lo seguiremos defendiendo la necesidad

pasen a este parlamento sin otro objetivo que defender una fiscalidad más justa más progresiva más igualitaria y defender la igualdad del conjunto de los ciudadanos gracias

muchas gracias señora presidenta yo no sabía que todos ustedes envidiaban tanto a mariano rajoy porque era mucho más progresista que ustedes

porque propone una subida fiscal inferior no me extraña que usted esté envidioso del señor mariano rajoy pero oiga atrévase a traerlas aquí plantéelas aquí no se quede corto

solo por recordarlo ustedes han pasado por el gobierno de españa dos veces la primera la dejaron como un solar y hubo que pedir un crédito según llegó el señor aznar para pagar las pensiones

un socavón que no es que no había para pagar las pensiones no había ni para pagar a los funcionarios y desde el minuto uno

no incrementa el crecimiento económico no favorece a la gente

y todos ustedes pidiendo que españa pidiera el rescate sí hace un año

que nos rescatará europa sí ustedes los primeros estos señores y todo el mundo diciendo que había que pedir el rescate bueno pues hoy con esas medidas que al señor maneiro no le gustan la prima de riesgo en vez de seiscientos está en doscientos

y parece que se empieza a crear empleo siento que le moleste tanto a usted siento que le moleste tanto pero también sabemos que para ayudar a ese crecimiento

y aquí se viene a proponer tarde y mal medidas que van en la dirección contraria de donde tiene que ir la economía que es lo que hemos dicho desde el principio señor pastor

y en esta comunidad autónoma que ha bajado las pensiones el suyo

en españa y aquí que ha bajado el sueldo de los funcionario el suyo

el suyo la legislatura pasada aquí entonces no me venga a hablar aquí de recortes ni de nada por favor seamos un poco serios que han estado hablando hasta antes de ayer recortes sociales los suyos

o a los funcionarios señora gorospe no sé cuantos funcionarios hay que ganen más de

pagan hipotecas y aportan a fondos de pensiones y a esos

y a los trabajadores que están en la misma situación también así que no nos hagamos trampas en el solitario

nos dice usted que a bildu no le gusta lo que ustedes presentan supongo que a nadie le gusta que le copien pero que le vamos a hacer ese

nuestro yo le estoy diciendo que lo que ustedes proponen hoy está vigente en gipuzkoa con alguna matización como se lo he dicho en los tramos en las rentas de capital y en el impuesto sobre sucesiones en la cuantía exenta

le voy a aceptar al señor gatzagaetxebarria que es que el partido nacionalista vasco

pleno pasado por lo tanto el partido nacionalista vasco

especialmente a los que ya pagamos y no se lo voy a discutir para qué le voy a discutir a usted eso si usted me dice que esta es la suya pues la suya yo no le voy a no seré yo que le digan a usted cuál es su propuesta fiscal nos ha quedado claro que esta es su propuesta fiscal desde luego no es la nuestra me dice que el pnv se mueve hacía delante

efectivamente ustedes se mueven hacía allí y no confunda que el partido popular o mariano rajoy haya tenido que tomar unas medidas que ha dicho desde principio que no le gustaban que no estábamos de acuerdo y que las modificaremos en el mismo momento que se pueda que va a ser prontito a que vayamos en esa dirección que sabemos que es mala

es posible que no me dice usted que el pelo vuelve a salir

yo no se lo voy a discutir hay casos en los que vuelve a salir se lo vuelven a arrancar vuelve a salir se lo vuelven arrancar pero vamos lo normal es cuando

se pone un peluquín parece que no se ha dejado los pelo por ahí pero todo el mundo sabe que es calvo

calvo se ha quedado y calvo sigue eso sí disimulando con el peluquín

ya le digo no es su caso porque me ha quedado claro después de este debate que esta es la propuesta del partido nacionalista vasco por lo tanto pues probablemente

que a mí me sorprende la melena que les veo señor consejero nos decía que las instituciones en este país siempre han llegado a acuerdos en materia fiscal y es cierto y el año pasado desde luego en bizkaia y en álava hubo un acuerdo como había habido siempre

es que en gipuzkoa eso fue imposible porque los socialistas se empeñaron en desarmonizar gipuzkoa porque la propuesta

porque tampoco hace falta tener tanta memoria estamos hablando de hace menos de un año señor pastor se le olvidó a usted trasladar esta propuesta a las juntas de bizkaia el año pasado esta tan buena sí sí se le olvidó

en fin es razonable quedarse calvo o tener olvidos pero bueno en este caso se le olvidó a usted trasladar esa propuesta tan buena que hoy casualmente

con lo cual yo no sé ustedes porque no se ponen la medalla parece que

lo que están proponiendo ustedes lo tienen rigiendo en guipúzcoa

y estos señores votaron radicalmente en contra pero como se mueven hacia adelante en ese movimiento están unos y en la flexibilidad

están los demás y señor consejero cuando se nos dice que el oct está para armonizar

este año le he oído a la representante del partido nacionalista vasco diciendo que el impuesto de patrimonio como se ha modificado recientemente no hace falta ver nada todos se han modificado recientemente el irpf sociedades todos todos los años llevamos modificando todo recientemente

y armonización señor consejero señores del gobierno vasco es que en todos los sitios hay que tener la misma fiscalidad

porque si por armonización se entiende eso pues a lo mejor tenemos que armonizarnos con españa porque yo tengo que recordar que la ley del concierto económico también exige armonización o aquí nos olvidamos todos de dónde estamos

tendremos que decir que la capacidad que nos da el concierto económico es meramente recaudatoria salvo que aquí alguien esté planteando otra cosa distinta

y si alguien plantea otra cosa distinta donde no tiene votos

que traslada sus propuestas fiscales porque no tienen ningún juntero en ninguna de las tres juntas y por lo tanto no puede plantear donde se aprueban las normas fiscales

no entiendo a ninguno de los demás grupos porque todos saben que si quieren modificar el concierto económico por la constitución se van al congreso de los diputados incluso si quieren modificar algunas propuestas fiscales que no les gustan

pidan bajarlo en el congreso de los diputados que lo pueden hacer todos tienen representación allí y todos los demás tienen representación en las juntas generales para proponer todas las modificaciones fiscales que están allí pertinentes entonces cuando aquí se nos está amenazando

entonces actuará la armonización fiscal qué quiere decir eso o ahora la política se hace señor pastor me decía no es un acuerdo de políticos y para políticos que estaba usted indignado oiga mire usted es un acuerdo de políticos y para políticos y se lo he explicado en la primera parte

ustedes están en la oposición al gobierno de españa y mirando a madrid permanentemente desde hace dos años

en esa tesitura en la que ustedes están a ustedes políticamente como políticos les interesa eso hacer oposición al gobierno de españa la empezaron hacer hasta desde del gobierno vasco por eso dejamos de apoyarles

pero usted se cree que le engaña a alguien diciendo que con este acuerdo los presupuestos que va a presentar este gobierno van a ser radicalmente distintos de los que trajo en marzo sí en qué cuantía en qué cuantía en mil quinientos millónes de euros o en los seis mil quinientos millónes de euros de más que según ustedes y este acuerdo

parece que no da por lo menos de momento a lo mejor el año que viene consiguen dar un paso más miren si de verdad tienen interés

para mejorar la fiscalidad de los vascos por supuesto que la fiscalidad es para redistribuir la riqueza por supuesto

pero si la fiscalidad que tenemos hoy es básicamente la que han votado ustedes desde hace treinta años en el

del irpf de madrid del resto de españa se olvidan ustedes que aquí nunca se trasladó

aquí nunca se trasladó porque ustedes se opusieron por lo tanto tampoco pueden comparar mucho unos datos con otros en cualquier caso

pues evidentemente saben en qué dirección nos vamos a mover nosotros en los sitios pertinentes donde evidentemente se van a aprobar las normas forales fiscales que es en las juntas generales y donde nosotros como he dicho desde el principio

hemos planteado en la de álava donde podemos plantearlo la reforma que nosotros proponemos para los alaveses y los demás

es el menos común de los sentidos pero dicho esto esango diot